egiteko eman den errege dekretua irakurtzeko tiene la palabra el señor secretario primero para proceder a la lectura del acuerdo del pleno del parlamento por el que se designa lehendakari al excelentísimo señor don iñigo

en el que se procede al correspondiente nombramiento honako hau egiaztatzen dut eusko legebiltzarrak bi mila hamaseiko azaroaren hogeita hiru

ehun eta hirurogeita bost certifico que el pleno del parlamento vasco en sesión celebrada los días veintitrés y veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis y de conformidad con lo dispuesto en los artículos ciento cincuenta y dos punto uno de la constitución

cuatro y cinco de la ley siete barra mil novecientos ochenta y uno de treinta de junio y ciento sesenta y cinco del reglamento del parlamento vasco

madrilen bi mila hamaseiko azaroaren hogeita bostean real decreto quinientos cuarenta barra dos mil dieciséis de veinticinco de noviembre por el que se nombra presidente del gobierno vasco a don iñigo urkullu renteria de conformidad con lo dispuesto en los artículos ciento cincuenta y dos punto uno de la constitución

a don iñigo urkullu renteria elegido por el parlamento vasco

de dos mil dieciséis dado en madrid el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis

hartuko da acto seguido se procederá a la toma de juramento que se efectuará bajo el árbol de gernika símbolo universal de libertades

lehendakariak bere sinestei jarraituz eta berak hala erabakita zina egingo du el lehendakari de acuerdo con sus convicciones y propia decisión va a prestar el juramento apal apalik

el secretario primero va a proceder a la lectura de los artículos veinticuatro y treinta y tres del estatuto de autonomía

artículo veinticuatro uno los poderes del país vasco se ejercerán a través del parlamento del gobierno y de su presidente o lehendakari artículo treinta y tres uno

dos el presidente designa y separa a los consejeros del gobierno dirige su acción

tiene la palabra el lehendakari del gobierno vasco para proceder a la toma de

por voluntad del parlamento vasco prestado el juramento

así como de la condición de representante ordinario del estado en su territorio que cumpliré con lealtad a la corona y respeto a la constitución el estatuto